la ley de elecciones al parlamento vasco fue aprobada en mil novecientos noventa y que desde entonces en sus casi treinta y cuatro años de vida ya ha sido objeto de cuatro modificaciones la que planteamos hoy la quinta modificación responde a tres objetivos

de género discapacidad y contención de gasto además

de las elecciones e introducir en el articulado las modificaciones necesarias y las adaptaciones derivadas de los últimos cambios que se han producido en la ley orgánica de régimen

voy a citar a alguna de las modificaciones más significativas a este proyecto de ley

el hecho mismo de votar en este proyecto de ley se proponen varias modificaciones por una parte en la referencia en el artículo ciento siete se establece que sean los y las votantes

en segundo lugar que los y las votantes que residen de forma permanente en el extranjero puedan ejercer su voto de forma presencial con las urnas que se coloquen al afecto la ley en su nueva redacción también en el artículo ciento treinta y dos bis propone la regulación del voto por correo para aquellas personas que

temporal por cuestiones de estudio o por cuestiones de trabajo pero también aquellas personas que están desplazadas por razones de turismo

esta propuesta de modificación de la ley aclara aspectos nuevos de las circunstancias que hacen que un voto sea considerado nulo se trata de aspectos muchos de ellos que ya venían siendo

pero que hasta ahora no se habían introducido en el texto de la ley con relación al derecho de sufragio pasivo en el artículo cuatro se modifican parcialmente

con relación a este tema la nueva regulación tiene en cuenta la diversidad de las entidades que forman parte del sector público de la comunidad autónoma del país vasco así por ejemplo a partir de la modificación de la ley no podrán presentarse como candidatos o candidatas aquellas personas que ocupen

en e i te be en sus sociedades o en sus medios de comunicación

altos cargos de las sociedades públicas y de las sociedades mayoritariamente participadas por estas por otro lado también se clarifica el alcance

a los ocupantes de puestos funcionariales que corresponden a libres designaciones como es el caso de subdirectores o subdirectoras o de delegados y delegadas

la nueva ley por otra parte también refuerza la administración electoral al fortalecer la capacidad o la facultad unificadora de la doctrina de la junta electoral de la comunidad autónoma ante los acuerdos de las juntas electorales territoriales o bien

se determinan claramente los plazos de resolución de los recursos en vía

y se contempla la labor auxiliar de los servicios informáticos del parlamento vasco y la junta electoral de la comunidad autónoma en este apartado general de refuerzo de la administración

importes de las sanciones a imponer por infracciones electorales todo esto se recoge en el artículo veintinueve y concretamente en el apartado j

aspecto que no estaba anteriormente contemplado en la ley en la formación de mesas electorales se amplía la edad hasta los setenta años para poder formar parte de una mesa electoral sin que ello suponga un deber exigible a estas personas

de forma motivada y resumida las causas por las que alguien que no ha aceptado las excusas o las dispensas para ser miembro de la mesa

aspecto se recoge en el artículo cuarenta y cuatro y otras de las modificaciones

campañas electorales de las instituciones públicas en periodo electoral solo podrán realizarse aquellas que resulten imprescindibles para salvaguardar el interés público

el voto podrá seguir haciendo campañas informativas sobre los aspectos relacionados con el hecho con el ejercicio de votar pero no campañas directas para incentivarlo también se establecen nuevos límites para las campañas precampañas de los partido políticos

y también se incorporan las reformas de la ley orgánica de régimen electoral general sobre utilización de los medios de comunicación tanto públicos como

proyecto de modificación de la ley de elecciones al parlamento vasco las modificaciones contribuyen a minorar los gastos electorales al limitar la publicidad y propaganda electoral al periodo propiamente de campaña electoral y a esto hay que añadir una reducción prevista del veinte por ciento del gasto de las candidaturas en la difusión de la propaganda mediante

de lo que corresponde a la campaña electoral con relación a la contención del gasto electoral dos aspectos que se recogen en la disposición transitoria primera por una parte la congelación de las cuantías de las subvenciones electorales a las formaciones

y por otra se proponen medidas que suponen una disminución del quince por ciento sobre la cuantía autorizada de límite del gasto electoral de las candidaturas esta reducción del quince por ciento que ahora se propone también se aplicaría a las primeras elecciones que se celebren a partir de este momento

en otro orden de cosas también se recogen acciones positivas en favor de la mujer algunas de las modificaciones propuestas por ejemplo son los motivos o se recogen motivos nuevos de dispensa para acudir

de la mesa electoral estamos hablando de los periodos de gestación y de lactancia y también se ha aprovechado en esta ocasión la modificación de la ley para revisar exhaustivamente la propia redacción del articulado de la ley y adaptar la redacción a una utilización correcta del lenguaje de género

más proactiva de personas que tienen discapacidad auditiva o visual en todo el proceso electoral tanto vayan a participar como miembros de la mesa o bien en el mismo ejercicio del derecho al voto por una parte se abre el camino para la posibilidad de regular el procedimiento que facilite la participación de personas que tienen discapacidad auditiva en las mesas electorales

y por otra parte también se prevé el establecimiento de medidas para que las personas con discapacidad visual puedan ejercer el derecho a sufragio de un modo personal y accesible

en los últimos comicios se contemplaron medidas tendentes a promocionar la participación directa y personal de los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad en los procesos

que posibiliten que personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto en igualdad de oportunidades

modificaciones planteadas se establece que previo informe favorable de la junta electoral se autoriza al gobierno vasco a realizar demostraciones y pruebas piloto con

otros sistemas de escrutinio u otros sistemas de gestión de la mesa electoral también se proponen medidas concretas

puedan descargarse directamente electrónicamente desde la página web de procesos electorales del gobierno vasco todos estos aspectos se recogen en el artículo ochenta y ocho y en

que proponemos en este proyecto de modificación de la ley de elecciones al parlamento vasco proyecto que fue aprobado en consejo de gobierno el trece de mayo de dos mil catorce

eta azken finean herritar guztiei hauteskunde eskubideak bermatzea las modificaciones propuestas por tanto ahondan en el ejercicio de garantizar que la ciudadanía

con procesos electorales transparentes seguros y objetivos

más representativos a los cargos representativos electorales en esta ocasión las modificaciones propuestas buscan plasmar a nivel electoral las políticas del gobierno en materia de género discapacidad y de ajuste de gastos

momentos en esta situación económica en la que vivimos por todo ello confío que en este proceso de debate que se abre hoy este proyecto de ley este proyecto de modificación de la ley de elecciones al parlamento vasco como digo sirva para fortalecer los consensos que faciliten su aprobación

sí muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos visto el contenido del proyecto de ley de quinta modificación de la ley de elecciones al parlamento vasco que nos presenta el gobierno comprobamos que al margen de que se incluyan determinados cambios legales que a nosotros nos parecen interesantes y compartimos

que se pudieran incluir es decir si hacemos un análisis de lo que se propone en esta modificación concluimos que hay determinadas modificaciones legales que el gobierno ha decidido

para incluir esos aspectos que en el pasado upyd ha defendido en esta cámara a través de distintas iniciativas parlamentarias siempre a través de proposiciones no de ley es decir que el gobierno vasco desaprovecha una magnífica oportunidad para mejorar la ley en profundidad y no solamente en parte

general los cambios legales que se propongan y las nuevas leyes que se elaboren en cualquier tipo de materia deben tener como objetivo primordial ampliar los derechos de los ciudadanos y garantizar más transparencia más participación

más igualdad y más democracia y este proyecto de ley no lo hace o no lo hace del todo o solo en parte y por lo tanto desaprovecha una magnífica oportunidad que nosotros hemos querido poner de manifiesto a través de la presentación de esta enmienda de totalidad

proyecto de ley introduce algunas modificaciones que nosotros consideramos

pero deja fuera otros asuntos que nosotros consideramos absolutamente primordiales si nos centramos en la materia electoral que es la que este proyecto de ley aborda debemos señalar que sus objetivos principales deberían ser incluir medidas que faciliten e impulsen la participación ciudadana en la regeneración democrática del sistema garantizar una mayor igualdad de voto del conjunto de los ciudadanos es cierto que para modificar la distribución de escaños entre los territorios históricos o incluso para implantar la circunscripción electoral única que nosotros hemos venido defendiendo en el pasado habría que modificar

como principio también me parece interesante defenderlo también en el pleno de hoy

entre los argumentos que nosotros hemos planteado en esta enmienda de totalidad ya sabemos que efectivamente haría falta

en fin creo que ese es un objetivo que deberíamos alcanzar cuanto antes si se quiere y si hay voluntad política podría modificarse esa distribución de escaños

con el objetivo de que el voto de cada uno de los ciudadanos valga exactamente igual y

o luchar con más contundencia contra la corrupción política y devolver a los ciudadanos el control sobre la acción

en este proyecto de ley sin embargo visto el contenido del proyecto de ley de quinta modificación de la ley de elecciones al parlamento vasco

y se posponen algunas medidas que son en nuestra opinión indispensables de poner en marcha de manera urgente es decir se desaprovecha una magnífica oportunidad para incluir determinadas medidas se deja pasar voluntariamente esta oportunidad

más allá de que determinadas medidas incluidas en este proyecto de ley puedan ser apropiadas determinadas cuestiones técnicas una serie de cuestiones que inciden en la formación de las mesas

en la publicidad y propaganda electoral durante la precampaña y campaña en la difusión de información electoral en los medios de comunicación privados en el desarrollo de la votación y del escrutinio y en la concesión del segundo adelanto electoral entre otras relacionadas con

y contención de gasto sin embargo se decide no incluir otras que son de extraordinaria importancia y que en nuestra opinión no pueden tales como una modificación legal que permita la inclusión del sistema de listas desbloqueadas una modificación legal que exija que el número uno de la lista de cada candidatura haya sido elegido por el sistema de primarias una modificación legal que impida que imputados por corrupción política puedan ir en listas electorales una modificación legal que obligue a los partidos políticos o coaliciones electorales al cumplimiento de una serie de

relacionados con la publicación y transparencia de entre otros sus presupuestos ordinarios sus cuentas anuales y sus presupuestos de campaña o una modificación legal que impida que junteros concejales o alcaldes puedan simultanear esos cargos con de diputado autonómico creo que estos son asuntos relevantes que el gobierno tendría que haber incluido en esta modificación legal nada de esto se propone por lo que consideramos que se deja pasar voluntariamente una oportunidad para impulsar reformas de calado

de ciudadanos está exigiendo es por esto que nosotros hemos decidido presentar una enmienda de totalidad y es por esto que le décimos al gobierno que nos presente

planteamos en nuestra enmienda de totalidad para que luego en los trámites posteriores en la ponencia y en la comisión podamos debatir con el resto

lo cierto es que muchas de estas propuestas que nosotros hemos recogido en esta enmienda de totalidad las hemos defendido en el pasado casi siempre a través de proposiciones no de ley y cuando hemos planteado estas propuestas a través proposiciones no de ley ha habido grupos que

estas iniciativas que no había que presentar estas iniciativas a través de una proposición no de ley sino que era mucho mejor hacerlo a través de una proposición de ley bien

todo lo que usted plantea o muchas de las cosas que usted plantea son ciertamente interesantes y suponen un avance sobre otras cuestiones que usted plantea

impulsar determinadas modificaciones pero queremos también que se hable de todas estas cuestiones que nosotros hemos planteado en nuestra enmienda de totalidad porque en fin creo que es el momento adecuado para introducir todas estas cuestiones ya digo que imputados por corrupción política

en listas electorales que concejales o alcaldes no puedan ser parlamentarios vascos es decir que no puedan simultanear ambos cargos en este punto defendemos en fin una persona un cargo público no solamente una persona un sueldo sino una persona un cargo público o que los partidos políticos o coaliciones electorales

y sus presupuestos y sus presupuestos de campaña que todas estas cuentas anuales y estos presupuestos también se publiciten a través de las correspondientes webs o la introducción de listas desbloqueadas que creo que es una reivindicación que la ciudadanía está pidiendo en los últimos tiempos cada vez con mayor interés y desde luego posibilitar el voto electrónico en fin reflexionar al menos sobre la posibilidad de que los partidos políticos

elegir a sus cabezas de lista a través de primarias y desde luego avanzar para que haya una mayor igualdad de voto

haría falta la modificación del estatuto de gernika pero en todo caso nosotros pensamos que es interesante volverlo a recordar

determinadas leyes como el estatuto de gernika en fin esto podría hacerse si hubiera

de todos los grupos parlamentarios por lo tanto de la misma forma que todas estas cuestiones las he defendido a través de proposiciones no de ley creo adecuado

volver a recordarlas volver a ponerlas encima de la mesa para ver si cuanto antes podemos debatirlas y llegar a los acuerdos más amplios posibles para tener
la mejor ley electoral posible que al fin y al cabo de eso se trata nada más y gracias eskerrik asko

señor lehendakari señoras y señores consejeros y consejeras muy brevemente señorías vamos a votar en contra de la enmienda a la totalidad planteada por el grupo parlamentario

no por estar en contra del contenido de la enmienda a la totalidad sino por la contradicción que supondría votar a favor de una enmienda a la totalidad que contiene aspectos que precisamente

estamos convencidos que son los que se deben de debatir precisamente en torno

extraño y parece extraño que echando en falta aspectos

hurtemos el debate y hurtemos la posibilidad de incorporarlos

de estrategia parlamentaria presentar una enmienda a la totalidad puede tener sentido pero no a efectos de lo que usted propone señor maneiro porque ya le digo

saliera adelante este parlamento no tendría la posibilidad de tener una ley como la

mejorada o compartida por los grupos parlamentarios por lo tanto yo ya le digo

pero no práctico debatamos incorporemos entre todos

que consideramos que sobren e intentemos consensuar un texto mejor de lo que se ha planteado en su caso en todo caso un texto compartido muchas gracias

gracias señora presidenta señorías comenzaré anunciando que los socialistas vascos vamos a votar en contra de la enmienda a la totalidad

reformar la ley de elecciones al parlamento vasco para actualizarla para mejorar la misma para afinar sus contenidos también como usted ha dicho para adecuarlo a los cambios legales ya realizados en la normativa básica

adecuar esta ley al nuevo tiempo establecer más garantías más participación ciudadana reforzar la democracia más transparencia establecer más controles más límites en la gestión de las campañas electorales y también vamos a votar en contra porque queremos que esta modificación

autonómicas para que entre en vigor y por eso vamos a votar en contra de su proposición de su enmienda y lo vamos a hacer también porque

cuando estábamos en el gobierno presentamos una propuesta de modificación de esta ley que es muy similar a la que ahora presenta el gobierno y aunque por falta de tiempo no se puedo tramitar hay que reconocer que este texto que hoy nos presenta el gobierno aunque con dos años de retraso porque podían haberlo mucho antes porque es muy similar

el gobierno socialista siendo el mismo texto o muy parecido nosotros vamos a ser coherentes y vamos a seguir apoyándolo para que se tramite en este parlamento se debata

una buena ley nosotros somos coherentes con lo que hemos hecho en el pasado y sorprende que siendo insisto una ley muy similar a la que el gobierno socialista usted en aquel momento señor maneiro no presentara enmienda a la totalidad y ahora presente enmienda a la totalidad yo me gustaría que

da la sensación que usted lo que pretende es que el gobierno haga el trabajo que usted tiene que hacer como parlamentario porque si a usted comparte que es necesario la ley como lo comparte en la exposición de motivos de su iniciativa comparte que

lo que no puede hacer es pedirle al gobierno que haga los deberes por usted parece razonable que en todo caso usted a través de la vía de enmiendas presente las enmiendas sobre todos los aspectos

para que en el trámite parlamentario podamos discutirlas como las de todos los demás para poder consensuar la ley creo que cada uno tenemos que hacer nuestros deberes y

cuando usted dice que esta ley este proyecto de ley no cumple las expectativas mínimas de la ciudadanía

quien interpreta el auténtico sentir y los deseos de la ciudadanía como si los demás

sus posiciones y sus reivindicaciones hay otro argumento además que usted mismo ha reconocido que no se puede

su aspiración de que los ciudadanos vascos según usted

sabe usted que esta cuestión no se resuelve en una ley electoral usted mismo lo ha dicho y por lo tanto en fin en la tribuna todo no vale

de la quinta modificación de la ley de elecciones al parlamento vasco y yo le invito a que en todo caso todos los aspectos que usted ha citado y que considera que no están incluidos en la propuesta del gobierno que haga lo que hemos hecho otros grupos parlamentarios que es presentar las enmiendas correspondientes

esa ley y para poder de verdad hacer la mejor ley entre todos porque partimos de un buen texto yo tuve el honor de presentar

este texto es muy similar y partimos de un texto que es mejorable pero que es un buen texto que permite desde el diálogo y el consenso de todos los grupos hacer una buena ley

por lo menos para los socialistas las mejores leyes electorales son las que se hacen desde el máximo diálogo y desde el máximo consenso estas son las que perduran

de las mayorías en cada uno de los casos en las cámaras parlamentarias y creo que esta ley muchas de las cosas que usted ha planteado las aborda prohíbe rigurosamente a las candidaturas de difundir propaganda en precampaña electoral refuerza con claridad

refuerza la reducción de gastos electorales a las candidaturas se reducen un quince por ciento los gastos como límite electoral se congela las subvenciones a los partidos se regulan mejor las campañas institucionales y se limita esa difusión

se procede a clarificar el voto nulo se toma medidas para facilitar la votación de ciudadanos con problemas

en definitiva son medidas que todos deberíamos compartir que es necesario incluir en la ley que es urgente

nosotros vamos a presentar enmiendas que también desde nuestro punto de vista mejoren el proyecto

que se apueste claramente por la igualdad entre mujeres y hombres garantizando el cincuenta por ciento de hombres y mujeres en las listas y además esto sea cremallera para que se garantice en todo momento esa igualdad

el voto electrónico pero que a diferencia del proyecto del gobierno se regule ese voto electrónico por ley y que sea el parlamento quien decida cuándo se introduce su aplicación en las elecciones en definitiva creo que tenemos base suficiente para hacer una buena ley y yo invito a todos también a usted señor maneiro a que

que en base al texto y a las enmiendas busquemos el máximo diálogo y el máximo consenso para hacer
la mejor ley muchas gracias eskerrik asko ares jauna

zuzenketa partzialen edo batzuen artean si pasamos por tanto al análisis de las propuestas concretas que subyacen en la enmienda de totalidad y que ha relatado el señor maneiro aquí y sin perjuicio del debate que tengamos posteriormente en comisión quisiera hacer las siguientes consideraciones dividiendo en cuatro grandes bloques

por una parte con respecto a la exigencia que plantea el señor maneiro de asegurar el valor igual del voto de los ciudadanos con independencia del territorio el texto de la enmienda de totalidad no concreta el sentido en la reforma propuesta aunque luego si ha adelantado o ha comentado el señor maneiro que apostaría por una circunscripción única la enmienda no dice

en tres circunscripciones pero como el propio señor maneiro ha reconocido en la tribuna

desde la ley electoral sin antes modificar el estatuto de autonomía por lo tanto lo procedente sería una proposición de ley de modificación del estatuto de autonomía y no aprovechar que el pisuerga pasa por valladolid para intentar colar como si esto fuera una ley ómnibus el número de tres circunscripciones una por territorio histórico está regulado en el artículo veintisiete punto dos del estatuto y la existencia del número igual de parlamentarios

pero como el señor maneiro a veces representa aquí aquel personaje de pepe isbert don erre que erre esta enmienda de totalidad tiene más que ver con eso que con el debate que estamos el segundo de los asuntos que se menciona

se refiere a la instauración de listas cerradas y desbloqueadas es cierto que existe en la opinión pública el debate sobre la posibilidad de instaurar listas abiertas o desbloquearlas frente a las comunes listas cerradas bloqueadas actualmente

esgrimen usualmente dos tipos de argumentos por un lado reforzar la participación ciudadana en el sistema político

y por otro reforzar el mandato representativo de los electos

a listas no bloqueadas y no cerradas en las elecciones al senado ya existen por ejemplo no ya listas cerradas y desbloqueadas sino listas abiertas sin que parezca ni se haya advertido que

históricos en ninguno de ambos objetivos buscados distintos a lo que sucede en otras elecciones lo usual es que el elector no altere la lista

por el partido de su elección y lo mismo podemos observarlo en el derecho comparado en aquellos países que tienen listas abiertas traigo esto a colación

en cuanto a asegurar una mayor transparencia y una mayor participación ciudadana en el sistema político no dependen tanto de la mera instauración de las listas abiertas sino de un conjunto de factores

especialmente por ejemplo así se trata de sistemas proporcionales o mayoritarios si las listas son uninominales o plurinominales así como otros factores exógenos

como el propio sistema de partidos la polarización de los partidos políticos y la cultura política de la ciudadanía en definitiva

al elector o a los electores las listas abiertas no garantizan per se

y la defensa a ultranza de las mismas como es conocido por experiencias

o a una dirigente política autoritaria y centralista en lo contrario o lo que sería la aplicación clara del viejo refrán castellano de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces la introducción de listas abiertas o listas desbloqueadas si bien puede presentar aspectos positivos no es en sí misma

ni está exenta de inconvenientes por lo que su introducción solo debería realizarse tras un proceso de reflexión amplio pausado

y que suscite sobre todo el consenso del conjunto de las fuerzas políticas no parece que con un voto a favor que vaya a tener

además para mayor abundamiento la introducción sin más de listas desbloqueadas supondría dejar sin efecto

en el momento en que abrimos la puerta a la modificación de las listas por parte de los electores cabe el riesgo cierto de generar desigualdad en la representación

la tercera cuestión de la que habla la enmienda a la totalidad es la inelegibilidad de los imputados por corrupción política en primer lugar

debería precisarse por razones de seguridad jurídica mínima el tipo de delitos a los que se refiere teniendo en cuenta que no existe el delito de corrupción política en el código penal pero además debe considerarse que tal causa de inelegibilidad

y supondría una pena anticipada de inhabilitación o suspensión que puede ser

por la comisión de un delito conforme al tribunal constitucional las causas de inelegibilidad deben estar tasadas e interpretadas restrictivamente teniendo en cuenta de que se trata de el ejercicio en derecho fundamental

sufragio pasivo la aceptación de la propuesta de upyd supondría por ejemplo que con una mera denuncia

se le privaría a este último temporalmente del derecho al sufragio pasivo impidiéndole concurrir a las elecciones solución

y a los derechos fundamentales es posible que una previsión legal de este tipo diera lugar a que se disparasen las denuncias y acusaciones falsas en el periodo pre electoral cerca de una precampaña electoral

de la competición a adversarios a rivales políticos en materia de las imputaciones y sus consecuencias

resulta más importante que los propios partidos establezcan normas internas respecto a las restricciones a presentarse

al mantenimiento y comportamientos claros y rotundos por parte de los partidos políticos la última cuestión que trae la enmienda de totalidad a colación se refiere a la inelegibilidad como parlamentarios vascos de concejales alcaldes o junteros

en la de totalidad habla de inelegibilidad y luego la correspondiente enmienda parcial se refiere a la incompatibilidad entre la condición de parlamentario y de dichos cargos locales o forales si realmente pretende establecer una nueva causa de inelegibilidad ello supondría

dicho así supondría que en cada proceso electoral se produjese un parón institucional en algunos municipios ya que todos los posibles candidatos que ejercieran de electos en el ámbito local o foral

a riesgo incluso de que luego no resulten elegidos

bases de régimen local y la loreg no existe causa de incompatibilidad entre ser parlamentario y alcalde o concejal

solamente al estatuto de los parlamentarios vascos máximo cuando el derecho comparado no existe un régimen de incompatibilidades tan severo propuesto para alcaldes y concejales no consideramos por tanto

sea preciso endurecer tales mecanismos de incompatibilidad que supondrían el trastorno de la vida municipal en muchos casos con la celebración de las elecciones al parlamento vasco

concejales por todas estas razones y sobre todo porque creemos que la legislación electoral es

y que por lo tanto debe partir cualquier modificación o su elaboración desde parámetros de amplísimo consenso entre los partidos políticos y como creemos que

es una base débil para la elaboración de un consenso amplio para la modificación de esta legislación básica es por lo que vamos a votar en contra de la enmienda nada más gracias eskerrik asko

sí gracias presidenta hombre no tiene mucho sentido esto de decir vamos a votar en contra porque únicamente usted va a votar a favor si ustedes votaran a favor ya no sería únicamente

el voto de un servidor el que sirviera para intentar sacar adelante esta enmienda sino que habría más parlamentarios por lo tanto esto no tiene demasiado sentido que por supuesto hay que buscar el máximo consenso

y alcanzar el máximo consenso en el proceso de debate posterior que se abre a partir de ahora tanto en la ponencia como en la comisión por supuesto que sí que este consenso es fundamental y que las leyes electorales en aspectos fundamentales no pueden cambiarse de un día para otro también estoy de acuerdo

las intervenciones más o menos positivas

sobre las que en todo caso nosotros estamos en disposición de debatir

como en la comisión lo cierto es que cuando defendió algunas de estas propuestas que nosotros hemos vuelto a defender a través de esta enmienda de totalidad

incluso en alguna ocasión donde algún representante de algún partido político incluso

al insulto para menospreciar las ideas que nosotros planteábamos bueno

a repetir creo que son propuestas todas ellas perfectamente democráticas perfectamente razonables perfectamente entendibles y perfectamente argumentadas que en los tiempos que corren pues efectivamente en mi opinión son las que vienen a defender una gran parte de la ciudadanía bueno el señor ares me echaba en cara esto de que nosotros digamos que este

bueno es nuestra opinión sobre la cuestión es nuestra opinión igual solamente lo piensa upyd esto pero yo creo que el debate en relación a las listas abiertas

en relación a que imputados o acusados formalmente por corrupción no puedan ir en listas en relación a que no se puedan simultanear varios cargos etcétera yo creo que esto está en la ciudadanía incluso alguna de estas propuestas yo le he escuchado al líder socialistas defenderlas recientemente

un cargo público y solamente un cargo público pero en fin en todo caso esta es una enmienda de totalidad eminentemente política por qué se plantea esta enmienda de totalidad pues porque a pesar de que este proyecto de ley introduce efectivamente y así lo he reconocido determinadas mejoras en la ley

fuera de esta modificación precisamente los asuntos que nosotros consideramos esenciales aquellos asuntos que consideramos más importante y por eso queríamos decirle al gobierno no estamos de acuerdo con lo que usted nos propone usted voluntariamente deja al margen determinados aspectos que nosotros consideramos esenciales por lo tanto vuelva a rehacer este proyecto de ley para que podamos debatir sobre esas cuestiones en todo caso

todas estas cuestiones las llevamos defendiendo desde el año dos mil siete y por lo tanto no tiene nada que ver con que determinadas formaciones políticas a irrumpir en el panorama político español o vasco no todas estas propuestas las llevamos defendiendo eso sí prácticamente en solitario dos mil siete pero en todo caso nosotros aceptamos que esta enmienda de totalidad se rechace efectivamente va a recibir un solo voto pero

la mayoría de ellas las hemos introducido a través de las correspondientes enmiendas parciales digamos que el señor iturrate ha querido debatir a fondo en relación a cada una de ellas ha adelantado la posición del grupo parlamentario nacionalistas vascos en relación a su oposición a las listas desbloqueadas o en relación a su oposición a que efectivamente un juntero un concejal o un alcalde no pueda ser a la vez parlamentario vasco bueno tendremos ocasión en la ponencia de ver efectivamente

con qué apoyos también cuenta usted en relación a todas estas cuestiones y nosotros esperamos avanzar en estas cuestiones que nosotros consideramos esenciales nos parece absolutamente

algún tipo de fórmula efectivamente segura jurídicamente para que imputados por corrupción política o acusados formalmente por corrupción política a ver si

no puedan ir en listas electorales con la máxima seguridad jurídica efectivamente y garantizando la presunción de inocencia pero creo que hay aquí posibilidad de que entre todos podamos avanzar y desde luego nosotros somos firmes partidarios de que junteros concejales y alcaldes no puedan simultanear sus cargos con el cargo autonómico esto lo llevamos defendiendo aquí y en otras partes de españa me parece que el cargo la responsabilidad de ser parlamentario vasco implica la suficiente carga de trabajo o implicaría la suficiente carga de trabajo

el que es efectivamente diputado autonómico no pueda ser también concejal

distintas en relación a que determinados parlamentarios vascos no pueden acudir al pleno porque tienen otras cosas que hacer

yo creo que sobre esto también podemos debatir nosotros pensamos que no se pueden simultanear ambos cargos que el que es concejal

o el que es alcalde de una determinada ciudad o un determinado municipio no puede ser a la vez diputado autonómico

parece ser que en los últimos tiempos hay algunos partidos políticos que quieren acompañarnos en este viaje en fin debatamos en todo caso

sobre la cuestión o también la posibilidad de avanzar en transparencia

a las elecciones que tengan transparencia en sus cuentas publiquen sus cuentas publiquen sus presupuestos

pero nos parece interesante que todas estas cuestiones puedan incluirse

igualdad de voto reconociendo y sabiendo que para alcanzar ese objetivo de que el voto de cada ciudadano valga exactamente igual independientemente del lugar donde viva

porque esta es una enmienda eminentemente política introducirla también en esta enmienda de totalidad

argumento que algún día también habrá que intentar

me quedo con lo positivo parece ser que hay una mayoría de grupos que quieren debatir sobre todas estas cuestiones nosotros vamos a proponer todas estas cuestiones están ya registradas evidentemente esas enmiendas parciales no es que hayamos dicho que no queramos debatir sobre estas cuestiones sino todo lo contrario estamos encantados y por lo tanto puesto que hay grupos que efectivamente nos han dicho que quieren debatir sobre todo esto nosotros estamos dispuestos a en la ponencia

defender todo esto con los máximos argumentos posibles para intentar convencer a una mayoría de grupos parlamentarios por lo tanto me quedo con eso con la voluntad de debate y acuerdo de una mayoría de grupos parlamentarios para alcanzar

señor maneiro cuanto más le escucho en esta tribuna menos razones

simplemente lo que haría es abortar la posibilidad de debate en esta cámara el problema es que usted

sobre cuestiones incluso que ni siquiera tienen nada que ver porque no se pueden incluir en la modificación de la ley electoral mire usted ha tenido la oportunidad de presentar todas las enmiendas que ha querido a este texto para discutirlas

y poder acordarlas muchas de las que usted ha enumerado aquí no están en las enmiendas que usted ha presentado ni siquiera algunas

por lo tanto usted no ha hecho bien sus deberes y está queriendo que los demás le resuelvan lo que usted ha sido incapaz de hacer y usted tiene la oportunidad de que aquellas cosas que usted llama esenciales y que no tienen capacidad que no tienen posibilidad de incluirse

a debate en este parlamento con propuestas concretas usted puede proponer que se discuta y se debata la modificación del estatuto

usted puede proponer en cortes que se modifique la ley de partidos

usted puede proponer en cortes generales modificar leyes de transparencia participación y también aquí en este parlamento por lo tanto no vale solo con hacer discurso usted ha querido simplemente aquí hacer discurso hacer un poco de populismo y demagogia intentar que los demás le hagamos sus deberes cuando usted no nos hace y mire no vale con predicar

señor maneiro hoy hemos escuchado otra vez unas frases que usted repite yo creo que semanalmente en

son perfectamente razonables perfectamente justificadas perfectamente entendibles y perfectamente argumentables ole

a prueba de bomba la suya siempre están perfectamente hechas perfectamente justificadas perfectamente argumentadas y las de los demás son las que adolecen de esas la verdad señor maneiro empiezo a pensar que usted con todo el respeto no tiene abuela

que ustedes aceptan que esta enmienda se rechace hombre

acepte que el resto de la cámara

entraría aquí a caballo y acabaríamos antes y me decía que veremos con qué apoyos

momento con veintisiete y las suyas de momento con una y luego en el debate parlamentario al que desde luego nosotros no nos negamos de hecho yo he empezado aquí haciendo eso debatiendo los argumentos de su enmienda de totalidad cosa que no sé si usted ha hecho tanto y

y que debate ahora señor maneiro debatir no es un sinónimo de convencer puede ser un camino un método el debate para el convencimiento

de estar por encima del bien y del mal y nos mira a todos repartiendo credenciales de democracia repartiendo credenciales

es cuanto menos un poco presuntuoso teniendo un parlamentario en esta cámara

ponerse en una especie de superioridad moral respecto a los demás y es cuando habla de

sin insistir en los argumentos que ya le he dicho del derecho básico al sufragio que tienen

reconocido a todas las personas usted tiene un grave problema señor o lo tienen el resto de cargos públicos con usted

y claro usted podría inhabilitar per se a un montón de candidatos de cualquier partido porque usted acusa

con remilgos usted en esta tribuna hablando de corrupción política

verdades verdaderas los casos de corrupción del partido nacionalista vasco y hablo del caso bermeo por ejemplo o del caso balmaseda por ejemplo

ni tan siquiera han llegado a llevar a juicio y con su cruzada por la limpieza estarían inhabilitados cometiendo una injusticia grave gravísima

de la reputación de compañeros míos de partido que algunos se sientan aquí y otros fuera y que después de que usted ha hablado de ellos como casos de corrupción ha quedado demostrado en los tribunales que no se trata de tal por lo tanto ya le adelanto que debatiremos todo lo que quiera de ese tema pero no estamos dispuestos a pasar

y para todo para todo hay que tener coherencias señor maneiro y que usted

hable de la democracia interna de los partidos políticos es que vamos es un poco risible el que tiene a la líder política

que más nos puede recordar las formas de hacer del señor stalin

sin ningún rubor ocupe el puesto que ocupe que venga dando en esta cámara a los demás lecciones de democracia interna es un sarcasmo nada más gracias eskerrik asko iturrate jauna

todas las modificaciones que se han realizado hasta el momento se hicieron con el objeto de adaptar la ley electoral vasca a la realidad política y social

sí gracias presidenta consecuencia del pacto fiscal firmado hace un año la mayoría de los impuestos en euskadi han quedado armonizados solo ha quedado fuera de esta circunstancia uno el impuesto de patrimonio denominado en gipuzkoa impuesto sobre la riqueza

fortunas por lo tanto ha quedado desarmonizado el impuesto que los expertos más aconsejan que esté armonizado para evitar deslocalizaciones y fugas de contribuyentes algo que según todos los datos ya está ocurriendo

lo cierto es que los expertos en fiscalidad señalan que si hay un impuesto que aconseja estar armonizado para evitar deslocalizaciones y fuga de capitales ese es precisamente el impuesto de patrimonio fundamentalmente por una razón la facilidad que tienen las grandes fortunas

su domicilio fiscal lo cierto es que el partido nacionalista vasco el partido socialista de euskadi y también el partido popular se comprometieron a dar ese paso

el único tributo que había quedado pendiente de armonizar creo por lo tanto que es un deseo compartido de una mayoría de grupos que tengamos cuanto antes un impuesto de patrimonio armonizado lo cierto es que a día de hoy hay dos modelos diferenciados por un lado el de gipuzkoa rebautizado como impuesto de las grandes fortunas y la riqueza y por otro lado

aprobado por el grupo socialista y por bildu en gipuzkoa los otros dos fueron aprobados por la mayoría conformada por el partido nacionalista vasco y el partido

cada uno puede tener su opinión en relación a esto o si incluso no debería haber ningún impuesto de patrimonio esta digamos que es una discusión

creo que lo que todos compartimos es la necesidad de tener un solo impuesto de patrimonio un solo modelo de impuesto de patrimonio vigente en cada uno de los tres territorios es lo mejor para todos los ciudadanos es lo que más nos interesa a todos y lo cierto es que si nadie lo remedia y nosotros en fin queremos remediarlo a través de la presentación de esta moción los tres territorios vascas mantendrán vigentes sus respectivos

el impuesto de patrimonio como el gran tributo pendiente de armonizar

aprobada hace un año y que supuso la equiparación del irpf impuesto de sociedades y el impuesto de sucesiones donaciones para remediar por lo tanto esta situación nosotros hemos planteado esta moción para ayudar a que esa armonización pueda producirse

dos puntos el primero de los puntos es un punto que ya se aprobó en este parlamente hace algunos meses forma parte de una presentada en su momento por el grupo socialista en fin consideramos interesante decir que este parlamento considera que euskadi precisa de un sistema tributario

y que responda a criterios de progresividad justicia y equidad tanto en la recaudación

un año en este mismo parlamento una iniciativa planteada por el grupo socialista y nosotros en la segunda parte de la moción lo que proponemos una fórmula que evidentemente puede ser discutida pero una fórmula para tratar de el impuesto de patrimonio cuanto antes y pueda ser aplicado este impuesto de patrimonio ya armonizado e igual en cada uno de los territorios históricos a partir del día uno de enero de dos mil quince y nosotros qué es lo que hemos planteado la constitución de una ponencia en este parlamento donde

la configuración de un impuesto de patrimonio que después las juntas generales de los territorios históricos en función de sus competencias pudieran aprobar antes

de esta moción es evidente y creo que es una moción sencilla es armonizar el impuesto de patrimonio porque

grupo político o cada partido político ha dicho en el pasado podemos estar de acuerdo en que todos los partidos políticos han venido reclamando esa indispensable armonización proponemos una ponencia parlamentaria que pudiera hacer

armonizador y después ya las juntas generales en base a sus competencias aceptaran o aprobarán las normas correspondientes para adecuar lo aprobado en este parlamento no defendemos la uniformización sino la armonización y no pretendemos en este caso dejar a las juntas generales de los territorios históricos sino hacer que el parlamento vasco pueda realizar también una determinada labor esa labor de intentar armonizar

parcialmente solo pero se ha hecho en el pasado por lo tanto esta es nuestra propuesta hemos podido leer durante todos estos meses infinidad de opiniones de determinados expertos fiscales en relación a la desarmonización fiscal existente y también

en gipuzkoa hay quien ha dicho que la situación va a ir a peor en gipuzkoa

del entorno ha habido quien ha dicho que es la tormenta perfecta y la pagarán las generaciones venideras aquí casi se desprecia al que genera actividad

tres o cuatro años el coste va a ser grande y los empresarios del territorio se irán ha habido también

comprometiéndose públicamente a hacer todo lo posible para que esa armonización pudiera darse cuanto antes pero

no se ha hecho nada no se ha adecuado esta situación y a día de hoy el impuesto de patrimonio sigue desarmonizado en fin creo que es un asunto

habrá que hacerlo y nosotros en fin lo que hemos planteado ha sido esa moción para que esta moción pudiera ayudar a lograr ese

fiscales vienen reiterando que si hay un impuesto que debe ser armonizado ese es el impuesto de patrimonio tanto

en los últimos tiempos han venido diciendo que había que armonizar el impuesto de patrimonio han venido diciendo que efectivamente tendría que conversar cuantos antes para que se produjera este hecho los meses han pasado

a esa situación nosotros con esta moción lo que hemos querido es ayudar a lograr ese objetivo ya digo no es cuestión de posicionarse

u otro no es cuestión de eso es cuestión de alcanzar el objetivo que creo que todos deberíamos compartir tener un solo impuesto de patrimonio

creo que esto sería interesante para el conjunto de los ciudadanos y por lo tanto esa es nuestra propuesta nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketarik

muchas gracias señora presidenta señor maneiro el partido popular nunca se ha comprometido

a modificar el que está vigente hoy en gipuzkoa y de hecho lo planteamos en las juntas de gipuzkoa en su momento con escaso éxito

no han sido coherentes y no han votado lo mismo en las tres juntas generales por eso no son iguales lo cual no quiere decir que esté desarmonizado y me sorprende mucho su discurso le voy a decir

euskadi precisa un sistema tributario armonizado con una presión fiscal global equivalente para todos los ciudadanos si usted nos recoge lo que ya dice

propia ley del concierto económico pues nos parece muy bien pero es que ya está no es que usted lo plantee es que

y dice lo siguiente los territorios históricos

mantendrán la presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del estado por lo tanto entre ellos y respetarán y garantizarán la libertad de circulación y establecimiento de las personas por todo el territorio nacional etcétera etcétera si usted considera

que es lo que nos ha dicho hoy que son las deslocalizaciones lo cual me sorprende que a usted le preocupen porque a usted no le preocupaban nada cuando por ejemplo aquí las juntas suprimieron las sicavs bueno dijeron como recaudamos poco por las sicavs vamos a subir los impuestos y usted aplaudía

pues al día siguiente desaparecieron todas y ya recaudamos cero se deslocalizaron pues sí pero eso es una decisión política

le apoya y al partido socialista que aprobó esa normativa no le preocupan las deslocalizaciones en gipuzkoa por este concepto qué quiere usted que le diga

es lo que la gente vota son los partidos que votan y demás pero le tengo que decir una cosa y le digo que se está olvidando usted del concierto económico porque es que el impuesto del patrimonio llámese como se llame que regula lo que regula

tiene características distintas en cada comunidad autónoma por ejemplo en madrid se paga cero

por igualar en el país vasco el impuesto de patrimonio si es que le preocupan de verdad las deslocalizaciones porque entonces tendríamos que ir al cero que es lo que planteó el señor rodríguez zapatero cuando gobernaba

que perdamos el tiempo en el parlamento vasco que creemos una ponencia que hablemos sobre esto y luego como usted mismo dice la propuesta se trasladará a las juntas generales para que hagan las modificaciones legislativas es decir usted nos dice

nos dice que perdamos aquí el tiempo que mandemos un texto después de no sé cuantos meses a las juntas generales que evidentemente en función de las mayorías que tienen aprobaran o no lo que quieran porque aquí no tenemos competencias para hacerlo según su propia iniciativa y yo qué quiere que le diga no voy a perder mucho más el tiempo y le anuncio que votaremos que no

presidenta señorías como se reconoce en la iniciativa

a través de este parlamento en lo que significa la organización fiscal dentro de él es cierto que se ha hecho con retraso es cierto que

costó que se abriera camino esto empezó a

del dieciséis de septiembre del año dos mil trece cuando suscribimos un acuerdo con el partido nacionalista vasco y con el gobierno vasco para hacer una serie de cosas entre otras un pleno de política fiscal que nos ha traído a donde estamos ahora fue en aquel veintiséis de septiembre del año dos mil trece donde se aprobaron treinta y dos resoluciones

abarcaban un montón de campos dentro de la política fiscal porque por un lado buscando tener más recursos se

planteaba la lucha contra el fraude fiscal con objetivos con instrumentos con medios se planteaba gravar más a quien más tiene ayudar a quienes están en la economía productiva se planteaba

armonizar hacerlo además de acuerdo a una ley que ya es del año mil novecientos ochenta y nueve es cierto que se ha tardado veinticuatro años esto con un poquito de fundamento de rigor de contenido pero es cierto que ya en estos momentos lo tenemos en marcha en aquellas resoluciones

hablábamos de concertar nuevas figuras tributarias fue un pleno con mucho contenido y de ese contenido se puede derivar en parte la preocupación que usted tiene o la iniciativa que usted plantea

que hoy nos proponga lo mismo que ya propuso

en un pleno de control cuando interpeló al consejero en relación a esto y digo que

porque si usted quiere hacer una labor de control sobre el gobierno algo que además lo que ha acordado este parlamento se lo facilita porque ha establecido cómo hacer ese control lo lógico es que

lo que no parece razonable es que de un control que tiene que hacer al gobierno termine poniendo deberes

que es un poco lo que viene a decirnos nos dice hagamos una ponencia para tratar este asunto

mire usted en la resolución cuatro en el punto seis

el compromiso interinstitucional de consensuar el órgano de coordinación tributaria a las eventuales reformas del resto de las figuras tributarias de nuestro ordenamiento atendiendo a las premisas básicas de coordinación armonización fiscal y colaboración mutua entre las instituciones de los territorios históricos es decir apartado seis de la resolución cuatro ya está hablando de como se hace la

que es el órgano de coordinación tributaria es que la resolución número cinco le dice que el parlamento vasco insta al gobierno vasco y a las diputaciones forales

lleven a efecto los trabajos técnicos precisos para proceder al desarrollo de aquella ley

en base a los siguientes principios generales la competencia para mantener establecer y regular el régimen tributario

históricos que corresponde a las juntas generales y diputaciones forales de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera de la constitución en el artículo cuarenta y unobigarrena del estatuto de autonomía del país vasco y el concierto económico de la comunidad autónoma del país vasco elemento esencial del núcleo intangible

de las competencias del gobierno vasco recogidas en la ley ochenta y nueve del treinta de mayo de harmonización colaboración y coordinación fiscal después

también vuelve a establecer que el órgano de coordinación tributaria tiene que elaborar un informe

también se dice que el gobierno vasco en un plazo determinado tendrá que proponer normativas para la harmonización es decir usted tiene aquí en la resolución número cinco que fue aprobada en este parlamento tiene el mecanismo para hacer el control y lo que le tiene que pedir al gobierno y lo que le tiene que pedir a las diputaciones

a mí me hubiera parecido bastante más razonable que usted hubiera venido diciendo que quiere que el impuesto de patrimonio sea de una determinada manera es decir que nos hiciera una propuesta política concreta y que usted dijera mire el impuesto de patrimonio hay que hacerlo así en el país vasco hay que hacerlo así

hay que hacerlo de esta manera hombre eso sería una propuesta de carácter político

por los grupos parlamentarios pero que usted nos diga que le tenemos que hacer una ponencia para darle sentido contenido o continuidad a sus iniciativas de control que no resuelve directamente con el gobierno esto no parece que es razonable y esto es

a proponer nosotros como socialistas ciertamente estamos muy orgullosos y satisfechos de haber podido mediante nuestra tenacidad conseguir que este parlamento haga política fiscal hable de política fiscal debata de política fiscal y que ese acuerdo político o de política fiscal esas resoluciones

desde quien tiene la competencia legislativa que son las juntas generales esto lo hizo un gobierno

insistencia tremenda el ponerlo de manifiesto encima de la mesa el que se hablara de ello el que finalmente concitara un apoyo suficiente mayoritario para tener que traerlo aquí fue en la presente legislatura donde se remató donde resolvió y bueno ya tenemos

está en marcha este parlamento ya ha dicho lo que tenía que decir sobre la harmonización fiscal y en todo caso lo que toca es hacer una labor de control y seguimiento al gobierno y al órgano de coordinación tributaria y a las diputaciones forales sobre cómo están cumpliendo estas resoluciones haga usted su trabajo por su cuenta el que le corresponde a usted y si nos quiere proponer algo a los nuevos parlamentarios háganos una propuesta

pero no de control al gobierno o de control a esas otras instituciones que este en todo caso es un asunto suyo y solamente suyo y por eso es por lo que vamos

cuál es el mejor de los distintos horretan bat nator gaur eztabaidatzen duguna

baina ez gatoz bat debemos tener un único impuesto esaten dozunean eta gero era berean esaten duzunean sin embargo

esandakoagaz bat nator que no sean iguales no quiere decir per se que estén desarmonizados

tributario armonizado no quiere decir que deba ser idéntico en todos los territorios históricos no me haga usted

que debemos tener un único impuesto idéntico por tanto no puede defender la identidad en un caso y luego decir lo contrario beste alde batetik zuk zure mozioan aipatzen duzu un sistema tributario armonizado

termino hori justifikatzea es importante

tributarias normativamente dispares no implica forzosamente que las presiones fiscales globales de los territorios históricos

la intervención armonizadora del parlamento vasco o justificaría la intervención armonizadora del parlamento vasco

la ley de armonización

de las distintas instituciones y no suplantar esa capacidad tributaria de los órganos forales competentes guk

al pnv sí le preocupan y mucho las deslocalizaciones

sí gracias presidenta cada uno de los grupos parlamentarios ha bajado

cada uno ha considerado y fuera el debate se ha acabado el impuestode patrimonio seguirá desarmonizado esta es la realidad

es decir en lugar de asumir que en euskadi existe un problema y es que el impuesto de patrimonio está desarmonizado y que algo habrá que hacer para solucionar este asunto cada uno lanza su mensaje y se olvidan del problema cómo

este problema nosotros hemos planteado una propuesta abierta a posibles enmiendas de otros grupos para intentar llegar a un acuerdo conjunto hemos incluso planteado unaponencia parlamentaria para que en esa ponencia parlamentaria hablemos todos los grupos y lleguemos a un acuerdo sobre cómo debería ser

no tiene por qué ser idéntico está perfectamente planteado

moción señora gorospe hay desarmonización en euskadi o no existe desarmonización en relación al impuesto de patrimonio sí existe desarmonización se quiere solucionar este problema pues yo veo que ustedes no quieren solucionar este problema en absoluto y encima acusan a un servidor de no realizar correctamente su trabajo cuando yo lo que he hecho ha sido venir aquí a intentar plantear una propuesta para solucionar este problema esto es lo que yo estoy defendiendo leíamos el día veintitrés de enero de dos mil catorce

para armonizar en euskadi el impuesto de patrimonio y cerrar el círculo

hacerlo conjuntamente a través de la ponencia que nosotros hemos propuesto si ustedes tienen otra fórmula mejor se puede plantear y se puede discutir pero ha pasado un año y el impuesto de patrimonio

porque no les interesa porque no se bajan de sus posiciones porque siguen haciendo los mismos discursos en relación a las mismas cosas una para hablar de cómo tiene que ser la fiscalidad o para defender un determinado impuesto

explicarnos qué es lo que dice la ley de concierto económico y lo que es desarmonización y lo que no es el impuesto de patrimonio está desarmonizado sí o no sí lo está

y planteamos una fórmula concreta pero ustedes no quieren

y no piensan en el interés general porque no interesa a todos al conjunto de los ciudadanos tener

lo más parecido posible y entiendo yo que este parlamento que para algo está o debería estar

básicos de ese impuesto de patrimonio me preocupan las deslocalizaciones señor damborenea y me preocupa la desigualdad fiscal ambas cosas

menos deslocalizaciones y para que haya más igualdad efectivamente si en otras comunidades autónomas como en madrid se decide eliminar el impuesto de patrimonio en madrid no está vigente este impuesto puede haber como consecuencia de ello deslocalizaciones cierto pero el hecho de que tengamos en euskadi tres impuestos de patrimonio distintos o dos básicamente amplia el problema agrava el problema hay más deslocalizaciones como consecuencia de que hay desarmonización fiscal en euskadi en relación

no se produce este hecho porque todos los expertos en la materia lo han dicho y lo han venido reiterando en los últimos tiempos y ha habido varios partidos políticos que han venido diciendo efectivamente hay que solucionar este problema no planteo yo quién tiene razón qué impuesto de patrimonio es mejor

el hecho de que haya dos impuestos de patrimonio básicamente distintos perjudica a todos lo están diciendo innumerables expertos y por eso hemos propuesto esta fórmula que al señor txarli prieto no le gusta

y se remite a la ley de armonización y a alguna cosa más pero lo cierto es que

el impuesto de patrimonio y por eso hemos pensado que esta fórmula era la más apropiada porque

podría ser la correcta podría haber planteado usted una enmienda de totalidad para avanzar en eso para llegar a algún tipo de acuerdo pero no les interesa no les interesa que salga adelante una iniciativa que pueda ser recogida

y positiva y por eso lo que hacen aquí es lanzar su discurso y

esta moción planteada claramente en positivo existe ese problema o no existe sí existe cuál es nuestra

esta moción que me parece bastante razonable porque lo que décimos es este parlamento puede hacer esa de armonizador pero respetamos las competencias de las juntas generales de los territorios históricos yo podía haber planteado otra cosa diferente

traiga usted un impuesto de patrimonio específico sobre el que podamos debatir qué me hubieran dicho entonces los demás grupos y usted mismo

puede plantear eso así por eso hemos planteado esta propuesta abierta una ponencia dentro de esta ponencia

concretan las propuestas de cada uno y de ahí sale una ponencia para que haya un impuesto de patrimonio armonizado que no tiene por qué ser idéntico esto es lo que nosotros queríamos aportar en positivo mover ficha en definitiva

el impuesto de patrimonio y cerrar el círculo lo que decía en los medios de comunicación el partido nacionalista vasco el veintitrés de enero de dos mil catorce

ustedes no quieren así el impuesto de patrimonio seguirá desarmonizado un año más esa es su aportación

señor maneiro o usted no quiere enterarse o no se entera

cuando yo le he leído el artículo tres del concierto económico lo que significa armonización fiscal y lo que significa desarmonización fiscal

a mí me extraña que alguien tan digamos centralista como usted en esta materia no se esté planteando la desarmonización en españa y le preocupe tanto que gipuzkoa tenga un impuesto del patrimonio que grave algo más

que hay empresas o empresarios que se puedan ir de gipuzkoa a dónde a álava o a bizkaia a lo mejor prefieren irse a madrid ya que se paga cero

ni a su partido y no lo han planteado en madrid ni en la comunidad

entonces yo no le voy a volver a explicar a usted que el que haya impuestos distintos no significa que la presión global

exactamente ni de lo que está hablando le preocupa la desigualdad

que sean distintos que haya normas distintas eso es lo que le preocupa eso es la desigualdad para usted que es lo que nos ha dicho ahora en la réplica pues no me haga caso a mí hágale caso al tribunal constitucional que lo tiene resuelto hace mil años

haga a los demás pero no nos cuente aquí

hay dos visiones y en esta cámara se lleva viendo hace mucho tiempo hay una visión de los que piensan que la política fiscal consiste en recaudar más para gastar más las administraciones y hay otros que pensamos que la política fiscal además sirve para fomentar la creación de empleo y atraer empresas no echarlas pero bueno nosotros somos minoría en esta cámara

para plantear esa política fiscal salvo los

y para mejorar la fiscalidad de los autónomos pero es evidente que de momento prima sobre todo en la izquierda la fiscalidad sirve para recaudar para gastar más no sirve para fomentar la creación de empleo y además no les preocupa pero también tengo que decirle una cosa si a los guipuzcoanos que son los que votan a sus junteros en las juntas generales votan

que no les importa que se deslocalicen empresas o empresarios

y hay que respetarla a mí no me gusta yo no estoy de acuerdo nosotros somos el único partido que hemos planteado modificar el impuesto de patrimonio llamado de grandes fortunas en gipuzkoa y nos hemos quedado sol pero usted estará conmigo

es lo que han decidido los guipuzcoanos incluidos los del partido socialista cosa que en álava y en bizkaia decidieron otra cosa muy distinta por cierto pero bueno es lícito más distinto todavía es en madrid que le repito que se paga cero

se vayan a madrid no no le he visto parece que le preocupa que se vayan de gipuzkoa

y le repito como no es cierto porque ni usted ni nadie ha planteado que en estos momentos no haya

no se puede hablar de desarmonización y cuando alguien lo plantee

y mientras tanto usted nos ha traído aquí una vez más fuegos de artificio

que hay que quitar el impuesto de patrimonio para equipararnos a madrid o que hay que subirlos todos para equipararlos a gipuzkoa cuál es su planteamiento

presidenta señor maneiro no se enfade no se disguste

solo queremos su felicidad y precisamente por ello cuando creemos que se equivoca se lo señalamos

digamos que esto es una ayuda es una ayuda parlamentaria usted necesita

solo y nosotros queremos de alguna forma acompañarle y entonces cuando viene aquí con nada le décimos oiga que se ha equivocado que no trae nada

y con buen talante y con talento intentamos explicárselo oiga si usted considera que hay un impuesto que está desarmonizado dirá dónde lo quiere armonizar porque usted lo que nos propone es que hagamos una excursión

pero bueno para qué si la forma de tratar problemas en la política hay variadas

no es necesario por cada problema plantear una ponencia no es necesario por cada iniciativa de upyd plantear una ponencia no es necesario por cada ocurrencia de upyd

es mojarse y decir como ya se le ha señalado aquí si quiere

o si quiere que haya el de gipuzkoa o si quiere que gipuzkoa tenga el de álava y el de

una propuesta concreta de impuesto de patrimonio se la valoraremos

enmiendas ni que le vayamos a hacer la ola sale aquí se enfada

pero si es que su iniciativa no tiene enmienda de ninguna forma no tiene ni tan siquiera propósito de enmienda o sea no sirve para nada esta es la realidad claro las cosas hay que tratarlas en esta cámara con un poquito de fundamento usted tiene

en la que le dice que el gobierno vasco en el plazo de cuatro meses tiene que elaborar

cuáles son aquellos elementos sustanciales que haya identificado como no armonizados

a efectos oportunos oiga pregúntele haga una pregunta dígale al órgano de coordinación tributaria si ha identificado algo al gobierno vasco si ha identificado algo

cada vez que a usted se le ocurra que nos tenemos que reunir y hacer un órgano

pretenda que le sigamos porque es que es bastante absurdo por lo tanto cuando quiera que

usted plantea aquí una propuesta fiscal concreta con contenido o lo plantea directamente en relaciones con los grupos políticos o lo plantea como le parezca más oportuno pero en fin una vez más ha venido a hacerse publicidad y se enfada

no le facilitamos la publicidad eskerrik asko prieto jauna

armonizados el resto de los impuestos consecuencia de la reforma fiscal armonizados ez

todos compartimos la necesidad de un solo modelo no defendemos la uniformización y no es cuestión de posicionarse a favor de un impuesto o de otro

a favor de un impuesto o de otro tanto usted como otros oradores lo han disimulado muy bien porque solo se ha referido única y exclusivamente en todo momento

de gipuzkoa así el impuesto de grandes fortunas de gipuzkoa es el culpable el ogro

según usted diferentes economistas y adituak esaten dugunez euskaraz expertos fiscales han dado esa lectura solo lee usted las lecturas de unos expertos fiscales como hacen otros oradores que han estado en esta sala

culpable el impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas de gipuzkoa

uno por ciento y se ha explicado activa pasiva en euskera en castellano ya no sé si explicarlo en chino mandarín

de que existe una cosa que se llama movimiento de las personas aquí hablamos solo de lo de gipuzkoa de los otros territorios por si acaso no sacamos los datos no vaya a ser que nos podamos comparar y es mucho mejor limitarse y

que los empresarios se van de gipuzkoa y se les trata muy mal y ya se pone sobre la mesa que

hace tiempo que vemos en este hemiciclo que existen dos maneras de ver la política fiscal la suya que eso sí lo ha definido

que luego ya ha dicho los de izquierdas que consiste en recaudar más para gastar más

de que repito definiciones pero es que señor damborenea es que usted no escucha no es que no es escuche es que no quiere escuchar por lo menos esta portavoz en ningún momento ha dicho

se limite a recaudar más para gastar más en ningún momento

ha entendido o ha querido entender porque les resulta cómodo

es una política fiscal que cada vez haga que el sector público sea más pequeño y

pero que queremos solo recaudar para gastar más nada más lejos de la realidad y usted lo sabe perfectamente y yo insisto

de lo mismo de la deslocalización y es

porque al final otro orador gorospe andreak ere esan du no es cuestión de posicionarse a favor de un impuesto u otro

de los contribuyentes los que han salido de gipuzkoa y ya no voy a empezar con los datos porque creo que no es el lugar ni el momento que ya lo hicimos en una comparecencia con la señora tapia y yo no voy a dar clases de economía porque ya se encargan otros de dar clases de economía aquí maneiro jauna bakarrik

no es cuestión de posicionarse de cual es mejor

que evidentemente nuestro grupo parlamentario el partido político al que represento

a cuál es mejor y cuál no es mejor eso no tenga usted ninguna duda maneiro

hay desarmonización o no insistía usted y realmente como decía prieto daba la sensación de que se había enfadado porque

lo que nosotros hemos procurado era justificar nuestra posición política en relación con su moción hay diferencias hay diferencias que deberían ser resueltas en el ámbito en el que corresponde y nosotros defendemos utilizar para ello la vía del acuerdo político

nuestro discurso nuestra intervención ha ido dirigida

no está justificada la intervención armonizadora del parlamento que es lo que usted está solicitando y básicamente nos hemos

en dos aspectos sin pretender dar ninguna clase de nada solo para justificar nuestra posición política en relación con este tema uno que no está justificado que usted no ha justificado que exista efectivamente

en la comunidad autónoma vasca una presión fiscal global de que no sea equivalente que no lo ha justificado que no está en riesgo la suficiencia financiera esos dos son los aspectos muy al hilo de su moción no creo que usted diga que nos hemos alejado de lo que era el contenido de la moción que usted presentaba el hilo de nuestro discurso usted ha dicho

artículo en el que el partido nacionalista vasco

hay que mover ficha y estamos moviendo ficha y estamos intentando por la vía del acuerdo político y donde corresponde

y respetando el ámbito competencial lo que pasa señor maneiro

abierta para más acuerdos una y mil veces a todos los representantes de este grupo parlamentario a todos los representantes del gobierno vasco

a todos los representantes del partido nacionalista vasco del cual somos representantes oirá una y mil veces hacer referencia referirse

como vía para ir avanzando en aquellos aspectos que tenemos diferentes elementos que nos pueden diferenciar qué es lo que pasa que usted solo está aquí que usted no está en ningún otro sitio más que aquí y por eso usted quiere trasladar sin suficiente justificación sin suficiente justificación y fundamentación

aquí pero no porque tenga razón no porque tenga razón en absoluto porque usted quiere estar presente por lo menos para poner el tema luego los demás que sigamos avanzando en esas ponencias que se constituyan porque donde

y vuelvo a decir que efectivamente nosotros décimos que hay diferencias diferencias que deben resolverse y me

recurriré a la comparecencia de arantza tapia porque hablando de deslocalizaciones y siendo ella

la máxima representante del departamento de desarrollo económico y responsable de la política industrial

con este tema y decía aunque solo fuera

los órganos competentes deberían tomar medidas y lo decía así de claro eso no quiere decir que esté justificada la intervención armonizadora del parlamento pero hay diferencias estamos preocupados y donde corresponde y por la vía política deberían darse pasos para avanzar

serán multados e identificados públicamente en el reino unido

sin embargo es un tema antiguo como la propia sociedad capitalista hoy se habla de que la devaluación de los salarios tiene que ver con la competitividad que es un término

relativamente reciente pero ya desde los albores del modelo de la sociedad capitalista hubo clásicos

malthus el propio marx que hablaban de la ley de bronce o de la ley de hierro de los salarios

que los salarios solo podían fluctuar en el nivel de subsistencia esto

sigue siendo cierto sigue siendo real porque según la encuesta de condiciones de vida elaborado por el inem en el dos mil trece el umbral de la pobreza

mientras que la cuantía neta del salario mínimo en ese año se sitúa

uno está por debajo del umbral de la pobreza españa quinta economía de la unión europea cuarta de la zona euro pero en materia de salario mínimo está

es decir que no se corresponde con su desarrollo económico el salario mínimo

no obstante hay quien piensa y quien sostiene con

que incluso esa retribución mínima debiera desaparecer de hecho hay países en la unión en los que no existe el salario mínimo es decir por lo tanto ese debate sobre la propia existencia del salario mínimo y cuál deber ser

su umbral es un debate permanente hay quien plantea que

ayuda a colocar a las personas sobre todo a aquellas que tienen menos cualificación sin embargo nosotros los socialistas creemos que la existencia de un salario mínimo

acorde con el desarrollo económico vendrá luego también el desarrollo de nuestra enmienda es un elemento clave para

siga abriéndose paso una determinada política de rentas que ayude además no solo por cuestiones de solidaridad interna y de cohesión sino también desde una perspectiva económica porque para que otra economista como keynes la crisis era de demanda es decir lo que hace falta es que las personas tengan capacidad y poder adquisitivo

efectivamente digamos la cuantía nominal del salario mínimo y otra cosa es el poder adquisitivo el poder de compra de esos salarios el salario real

en los últimos cinco años ha perdido cinco coma cuatro puntos de poder adquisitivo esta es la realidad

de un incremento del dos coma cinco por ciento cosa que el grupo parlamentario socialista propuso en el congreso con poco éxito también a pesar de que toda la oposición

ahora hablar de un incremento del dos coma cinco para el dos mil catorce es un poco extemporáneo porque el ejercicio está a punto de acabar sin embargo las centrales sindicales

que es necesario aumentar según su propuesta el doce coma cinco por ciento para el año dos mil quince

al objeto de ir alcanzando en fin unas cuantías que permitan tal y como plantea nuestra enmienda

del salario medio nacional que es verdad si tomamos el salario medio nacional español y el salario medio nacional vasco son distintos y

entonces entendiendo perfectamente la propuesta de euskal herria bildu creemos

seamos realistas pidamos lo imposible esta es la razón por la que

llegar a acuerdos con ustedes en este punto compartiendo de todas maneras la idea central y nuclear de que el salario mínimo interprofesional

forma parte también de la política de rentas tiene que estar debidamente retribuido y por supuesto no fluctuando en los niveles de subsistencia que es lo que

fue el consejo de europa el que interpretó esa recomendación de la carta social plantea lo del sesenta por ciento del salario medio nacional como equivalente pero también conviene tener en cuenta que el resultante de eso tiene que tener digamos una proporción con la renta per capita si se atendiera las peticiones que hacen los sindicatos comisiones y

no llegaría más que en todo caso al cuatro coma seis de la rentaper capita muy lejos todavía de países como francia o bélgica es decir que el recorrido todavía

los umbrales razonables para hacer realidad ese dicterio de la carta social interpretada en su momento por el consejo

respecto de señor maneiro upyd

la idea que subyace en su enmienda lo que pasa es que no hemos llevado a cabo ningún esfuerzo de transacción porque probablemente

enmienda y esa es básicamente la razón por la que no he atendido el ruego de buscar

en definitiva la cuestión de los salarios es una cuestión

a día de hoy sobre el hecho de que se mueve en los umbrales de subsistencia demostrado en este caso por el propio instituto nacional de estadística por otros estudios de la fundación del bbva de adecco es decir está muy por debajo esa devaluación también el propio salario medio nacional ha perdido poder adquisitivo y por lo tanto ponerlo en relación con algo que va perdiendo poder adquisitivo quizá no es

lo más adecuado pero es así como se plantea en la carta social es decir una referencia que permita fijar esos salarios mínimos

que estén muy por encima de ese umbral de la pobreza eso es lo que da cohesión a una sociedad eso es lo que además permite políticas económicas de activación lo que en otros lugares al otro lado del atlántico han servido políticas de demanda crear digamos incentivar

reactivarla por eso entendemos que es una combinación ideal entre lo que debe ser una política económica

con lo que debe de ser también lógicamente los principios de solidaridad de un estado social que se precie de subir esos umbrales

presidenta un debate ciertamente interesante el salario mínimo interprofesional tal y como se ha dicho fija la cuantía retributiva mínima que percibirá el trabajador es referida a la jornada legal de trabajo sin distinción de sexo o edad de los trabajadores sean fijos eventuales o temporales el valor que toma el salario mínimo interprofesional se fija cada año

y para la determinación del mismo se tienen en cuenta factores como el ipc la productividad media nacional alcanzada o el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional

el salario mínimo interprofesional vigente a día de hoy en españa podemos llegar a la conclusión que efectivamente este es un salario mínimo ciertamente ridículo y

el año dos mil trece lo cierto es que este último año ha sufrido una nueva congelación ya sufrió la congelación en el año dos mil once y también en el año dos mil doce y a través de estas medidas impulsadas por el gobierno de españa

en el ámbito europeo durante un año más por lo tanto el salario mínimo

en los seiscientos cincuenta y cuatro coma treinta euros al mes lo que equivale a veintiuno coma cincuenta y uno

euros anuales el salario mínimo considera catorce pagas anuales esa es por lo tanto la evolución

en españa congelación en dos mil once congelación en dos mil doce ridícula revalorización en dos mil trece y nueva congelación en el año dos mil catorce si echamos la vista a qué es lo que ocurre en países cercanos de nuestro entorno pues efectivamente españa está

polonia rumania o bulgaria por lo tanto los valores del salario

de nuestro entorno en españa el salario mínimo cubre el treinta y cinco por ciento del salario medio en países como francia cubre casi el cincuenta por ciento pero sin duda lo más importante es que la congelación del salario mínimo supone un recorte social y por qué es un recorte social la congelación del salario

o la escasa revalorización que ha tenido este salario en los últimos años pues porque el salario mínimo es la referencia de muchas prestaciones sociales y el salario mínimo determina las prestaciones de desempleo la cotización del subsidio de desempleo además de ser referencia en la renta de garantía de ingresos ese referente para embargos de sueldos y prestaciones además evidentemente de ser el salario de todas aquellas personas que tienen el salario mínimo como sueldo

y modificación de la negociación colectiva cada vez son más personas por desgracia las que únicamente cobran el salario mínimo las hay incluso que cobran menos surge como consecuencia de todas estas políticas que se han venido aplicando esa nueva clase social a la que solemos hacer referencia personas que trabajan tienen un trabajo

de mes y la congelación del salario mínimo tiene efectos negativos sobre el ahorro por la reducción de ingresos que deriva de su

congelar o disminuir algo que es mínimo tiene una severa gravedad el salario mínimo debería de estar blindado ante cualquier tipo de congelación o recorte algo que se ha demostrado imposible en los últimos años

desde el principio prácticamente en el punto de mira gubernamental en toda la política de gestión de la crisis mediante recortes sociales y restricciones presupuestarias

el salario mínimo ha perdido una parte de su carácter ya que desde dos mil once hasta ahora ha subido menos de cuatro al mes y ha perdido como aquí se ha dicho poder adquisitivo y es evidente la necesidad de que el salario mínimo recupere su objetivo recupere su cuantía

se ponga en valor su papel en la economía en fin por dignidad por justicia y también para reactivar la actividad económica y la propia economía asentar la competitividad del mercado y la estabilidad de la economía sobre los recortes salariales o sobre la congelación de los sueltos o sobre la congelación del salario mínimo

en vías de desarrollo pero no debería ser una medida puesta en marcha en países desarrollados es necesario por lo tanto corregir la situación actual a través de propuestas concretas que han de partir del gobierno y los agentes sociales y que deben ser controladas por el parlamento nacional que es quien tiene la competencia para

este tipo de asuntos nuestra enmienda opta

que precarizan las condiciones laborales y salariales y en definitiva agravan aún más la difícil situación a la que actualmente se enfrentan los ciudadanos

rechace contundentemente la última congelación del salario mínimo interprofesional impulsada por el gobierno de españa por ser una medida injusta regresiva contraproducente e indigna de un país que quiere equipararse a los países más avanzados de su entorno

la última propuesta planteada por el círculo de empresarios de reducir el salario mínimo interprofesional a los trabajadores sin formación por ser una propuesta injusta regresiva contraproducente indigna de un país que quiere equipararse a los países más avanzados por qué incluíamos este segundo punto en esta enmienda de totalidad pues efectivamente cuando se planteó esta iniciativa planteada por eh bildu justo en aquellos días escuchábamos al círculo

a los trabajadores sin formación y por eso consideramos interesante incluir también nuestro rechazo contundente a ese planteamiento del círculo de empresarios y planteamos también instar al gobierno de españa a incrementar progresivamente el salario mínimo hasta que pueda alcanzar niveles dignos y semejantes a la de los de los países más avanzados

que precarizan las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y en general que perjudican la vida del conjunto de los ciudadanos

a corregir los recortes impulsados durante los últimos años en la ley de garantía de ingresos y para la inclusión social y a fortalecer el propio sistema en lugar de debilitarlo evidentemente no vamos a votar a favor de la iniciativa original

pensada o basada en que euskadi es un país independiente y es obvio que euskadi no es un país independiente y que la competencia en este asunto del gobierno de españa por eso nos parecía apropiada no solamente nuestra enmienda de totalidad sino incluso llegar a algún tipo de acuerdo con el grupo socialista para

upyd efectivamente esto no ha sido posible no sé si el grupo nacionalistas vascos creo que no ha tomado la decisión de no votar a favor de ninguna transaccional que lleve la firma de upyd no creo que esto sea así no creo que estemos ante esta situación en todo caso y para que no haya dudas

a votar favorablemente la iniciativa del grupo socialista nos parece justa nos parece razonable y también porque compartimos los argumentos planteados por el señor itxaso